y luchar colectivamente y efectivamente urteetako borroka feministari esker

esto se puede reflejar claramente en el conflicto que actualmente se tiene con la patronal guipuzcoana en relación a las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de las residencias que en su mayoría como bien he dicho componen el noventa y siete por ciento de la plantilla

en este caso intereses ideológicos puramente de la derecha capitalista contra lo que promueve la diputación foral de gipuzkoa quien con el apoyo de la mayoría sindical propone destinar ocho coma dos millónes de euros para defender la igualdad y las condiciones laborales dignas y de calidad para las personas cuidadoras

y cuando lo hacemos suelen ser en condiciones más precarias cuando no en condiciones de esclavitud como es el caso de las mujeres trabajadoras del hogar y cuidadoras de personas dependientes mayoritariamente además mujeres inmigrantes que siguen sumando así precariedad a precariedad eta horretaz gain

se nos impone la maternidad como destino se nos exige un ideal

se nos infantiliza como ciudadanas sin capacidad de tomar decisiones y todavía se nos llama paranoicas cuando reivindicamos nuestros derechos

en hablar exclusivamente de crisis económica o de estallido financiero

que afecta a los parámetros básicos del sistema vigente políticos económicos sociales ecológicos alimentarios climáticos y de género las mujeres sostenemos la vida el planeta el mercado y la economía oficial y esto solo puede existir mediante el trabajo reproductivo y de cuidados desarrollado básicamente por mujeres

o del veinte por ciento como nos ha comentado emakunde no sé cómo pretende el gobierno vasco priorizar las políticas de igualdad tal y como promulga

como el de muchas otras formaciones políticas se queda en palabras solo en palabras y suponen un ataque frontal a las mujeres

dentro del gobierno en un lugar de capacidad con incidencia política real aunque lo más importante es la voluntad política de quien dirige y desde luego con los brutales recortes que se nos presentan la voluntad que ustedes muestran queda perfectamente reflejada y se contrapone a las reivindicaciones feministas

hemos sabido que esta responsabilidad volverá a recaer en el órgano encargado de las políticas de igualdad evidentemente nos parece correcto

porque según la anterior directora de emakunde no se disponían de los recursos económicos necesarios se puede partir de esta propuesta inicial para retomarlo

aunque insisto con un recorte de semejantes características es imposible impulsar políticas de igualdad

no nos sirven meras declaraciones de intenciones los hechos son los que avalan y reafirman aquello que supuestamente se reivindica y ustedes con este recorte se retratan perfectamente

para finalizar me gustaría comentar que mañana ocho de marzo día internacional de las mujeres saldremos a la calle para decir una vez más que este sistema nos oprime y nos discrimina

y que la lucha continúa queremos hacerlo uniendo nuestras voces a las de todas las mujeres comprometidas con un mundo sin patriarcado sin injusticias y sin dominaciones

mañana será un día de celebración pero fundamentalmente de lucha de lucha por todos los derechos pendientes

de derechos iguales y oportunidades conquistadas para todas y todos siguen existiendo situaciones de desigualdad de lucha para eliminar las diferentes causas de dominación de las mujeres por cuestión de raza sexo edad clases opción sexual e identidad de género

de lucha para gritar que no nos sirven soluciones parciales y medidas puntuales que intentan parchear el problema sin tocar el corazón del mismo de lucha para reivindicar que nuestro objetivo no es integrar a las mujeres en el modelo socioeconómico actual sino cambiar el modelo para que todas las mujeres seamos libres

queremos compartir el trabajo y decidir en qué es óptimo trabajar queremos decidir sobre lo que nos afecta sobre lo que queremos en definitiva queremos

betetze eta ebaluazioan la proposición no de ley que nos trae la señora urrea justifica un cambio organizacional apelando al hecho de que así se garantizaría el carácter transversal de las políticas de igualdad sin embargo es importante subrayar que el carácter transversal de las políticas de igualdad del gobierno vasco no dependen ahora tanto ya de la formulación del organigrama del gobierno cuanto de la voluntad política de aplicar el mainstreaming llamado universalmente la transversalidad de genero en la gestión pública es decir lo que hace falta es que el actual gobierno reconozca

todos y cada uno de los departamentos del gobierno vasco

en la planificación ejecución y evaluación de las políticas públicas

se aprobó el quinto plan de igualdad que introdujo como gran novedad el mainstreaming no como un eje sino como la metodología general de todo el plan reconociendo así la necesidad de abordar las políticas de igualdad desde la transversalidad de la perspectiva de genero fue el primer gobierno vasco y esto

que contó con unidades administrativas de igualdad en todos los departamentos en cumplimiento de la ley cuatro barra dos mil cinco para la igualdad

se desprende ya de las evaluaciones parciales del quinto plan correspondiente a la noveno legislatura ahora tendremos que tener el sexto plan correspondiente

un gran impulso en el carácter transversal de las políticas de igualdad del gobierno socialista los presupuestos se hicieron con perspectiva de genero y fueron desarrollados en muchas ocasiones por emakunde ya en cuatro departamentos el programa zaindu en sanidad concretamente se hizo para la formación del personal sanitario en aras de detectar

casos de violencia contra las mujeres el reconocimiento del trabajo realizado por las rederas el trabajo con las mujeres inmigrantes

los avances en el reconocimiento y apoyo al deporte femenino de alto nivel el plan concilia con el departamento de asuntos sociales y en fin

que el departamento de educación trabajó con esmero y con profundidad en múltiples programas para desarrollar la igualdad en la escuela y este es precisamente el punto clave es decir si arreglamos la fuente de la educación

serán medidas paliativas digo que en educación se desarrolló el programa nahiko para la igualdad en primaria beldur barik para la secundaria con eudel y emakunde se hicieron jornadas contra la violencia de genero

para con criterio de evaluación de igualdad de genero establecer los cursos necesarios se estableció una responsabilidad dentro de los berritzegunes y de los consejos escolares

y además se establecieron programas específicos y transversales

señorías entendemos que la actual configuración de nuestro entramado institucional en este momento no impide

he de coincidir con la señora urrea que a pesar de lo hecho todavía queda mucho por hacer muchísimo por hacer hay

hay escasa visibilidad todavía de las mujeres en los espacios de representación y aquí en la política todavía podemos tener un espejo pero no en la empresa no en el arte no en los museos

pero hemos de decir que emakunde es el único instituto de la mujer de nuestro entorno con rango de viceconsejería con un rango suficiente

al instituto en un lugar de privilegio para poder impulsar

que es el punto clave en el cual con toda seguridad coincidimos por tanto es importante ya con esta configuración institucional que

las prioridades de emakunde estén entre sus acciones otorgar esa importancia

y también es importante ver los recursos que el actual gobierno vaya a destinar

observaremos con mucho cuidado el próximo presupuesto la transversalidad señorías es fundamental para garantizar el desarrollo de las políticas de igualdad y la consecución de esa igualdad real entre mujeres y hombres de euskadi

la voluntad política la que impulsará esas unidades administrativas en cada uno de los departamentos que permitirán visibilizar

el tratamiento de género todas las realizaciones y objetivos a alcanzar he de decirles que elgobierno lópez

la dirección de violencia de género lo que fue un acierto y supuso

incremento de recursos financieros y personales en el ámbito de la violencia contra las mujeres hoy depende de emakunde y por lo tanto una buena parte de la propuesta ahí ha quedado realizada la violencia

y por lo tanto hay que tratarla y hay que neutralizarla con todos nuestros recursos esperamos

que entendemos será traído a la comisión de derechos humanos en breve y

el nuevo gobierno realice ese sexto plan de igualdad que nos permita a todos conseguir los objetivos en los que creo que coincidimos que es la transversalidad el mainstreaming

una igualdad en la que todavía queda muchos espacio para recorrer nada más y muchas gracias eskerrik asko

todas esas situaciones que eh bildu propone en su propuesta acaso no se gestionan y se desarrollan dentro de la presidencia del gobierno

acaso no se garantiza la transversalidad de esas políticas en todos los departamentos del gobierno vasco seis personas como hemos dicho antes representantes de la administración de la comunidad autónoma

las siguientes materias educación trabajo sanidad industria cultura y asuntos sociales

y la coordinación y seguimiento de los departamentos y organismos autónomos que componen el gobierno vasco así como la administración foral y local que también participan en la misma

no insertarán el punto de vista de género a la hora de adoptar desarrollar y evaluar decisiones públicas en sus respectivas áreas solo por coherencia

y aparte por la concienciación existente al respecto ya se da prioridad a este tema al tema de la igualdad el gobierno vasco lleva veinticinco años trabajando en ella

económica cultural y social del país vasco que se fija como objetivos la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación contra la mujer la promoción de las condiciones que faciliten la igualdad entre los sexos

y de derecho y ya tienen asignados los recursos presupuestarios necesarios que aunque la propia emakunde haya previsto que su presupuesto pueda verse reducido

y por supuesto que emakunde colabora con diferentes asociaciones de mujeres tal y como eh bildu pide para la interlocución política deben tener los agentes y la ciudadanía con el gobierno

a un acuerdo transaccional con el grupo socialista por pura coherencia política para qué cambiar algo que ya funciona y funciona bien que ya existe y por respeto real y profundo al organismo que lleva luchando veinticinco años por la igualdad entre hombres y mujeres en euskadi en todos los ámbitos de sus vidas

un organismo cuya labor transciende a las demás áreas del gobierno aplicándose las mismas y un organismo al cual mediante la transaccional animamos

me gustaría comenzar por mostrar nuestro acuerdo con el objetivo creo que compartido por todos

pero no compartimos ni el análisis de la situación actual ni los objetivos que señala el grupo proponente

referencias comunes para unión progreso y democracia nuestras referencias básicas son las políticas de la unión europea y naciones unidas en materia de igualdad desde la cuarta conferencia internacional sobre la mujer de pekín mil novecientos noventa y cinco

centrándonos en el marco europeo la igualdad es uno de los cinco valores en los que se fundamenta la unión europea de forma específica

es uno de los principios fundamentales del derecho comunitario

en garantizar la igualdad de oportunidades y el trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación basada

la carta de derechos fundamentales que tiene el mismo valor legal que los tratados refuerza el derecho a la no discriminación la unión europea

origen étnico o racial religión o creencias edad y orientación sexual asimismo los tratados prohíben la discriminación basada en la

pero también la unión europea nos indica literalmente que las mujeres comparten problemas comunes que solo pueden resolverse trabajando conjuntamente en colaboración con los hombres para alcanzar el objetivo común de la igualdad

en todo el mundo en esta línea upyd

de igualdad que termine con las discriminaciones que todavía hoy soportan las mujeres por el hecho de serlo

el elemento esencial de la democracia actual y una sociedad más justa nos compete a todos elemento central de la política actual de la unión europea es la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres dos mil diez dos mil quince de la comisión europea en él

han permitido mejorar la vida de muchos ciudadanos europeos y sentar las bases sobre las que ahora hemos de cimentar una sociedad auténticamente

a las mujeres y haciendo que muchas de las conquistas igualitarias hayan retrocedido incluso pero de ahí a considerar que la situación de las mujeres en nuestra sociedad

comunes queda mucho por hacer efectivamente pero se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas más allá del diagnóstico a nuestro juicio erróneo el grupo proponente nos situá frente al reto de la transversalidad de las políticas de igualdad elevando su rango competencial en el organigrama del ejecutivo vasco

de la unión europea de hecho por ser precisos la unión europea utiliza un concepto seguramente más ambicioso que la mera transversalidad

es la incorporación de la perspectiva de género a toda la acción política

lo esencial es que las políticas de igualdad no sean un florero políticamente correcto partiendo de la base de que los roles sociales son desiguales todavía en las sociedades actuales el objetivo del mainstreaming es superar las discriminaciones que sufren las mujeres

esa es la clave de incorporar esta perspectiva a la acción política en esa línea la comisión nos advierte y dice exactamente lo siguiente

violan derechos fundamentales además imponen una pesada carga a la economía y suponen un despilfarro de talentos por otra parte

puede aportar ventajas económicas y empresariales para lograr los objetivos de europa dos mil veinte tal como se dice estoy leyendo literalmente es decir un crecimiento inteligente sostenible e integrador es preciso utilizar el potencial y los talentos de las mujeres de manera más extensa y eficaz

integrante de la formulación de políticas de la comisión y también mediante procesos de análisis de impacto y evaluación la comisión se propone aumentar la base de conocimientos sobre la igualdad entre mujeres

esta línea upyd estaría de acuerdo en una propuesta de mayor peso de la transversalidad

que el grupo proponente nos propone en nuestra opinión lo más sensato nos parecería evaluar previamente las políticas de igualdad que se han aplicado en nuestra comunidad

emakunde ha tenido la responsabilidad de desarrollarlas y en general el gobierno vasco y su plasmación trasversal en los distintos departamentos

podríamos proponer cambios razonables que reforzaran la adopción de la perspectiva de igualdad en la acción política vasca

que es como se trabajan las políticas de igualdad en clave europea y en clave internacional nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

eraginkorragoa izaten saiatu behar dugu guztion artean por ello como decía hay que seguir actuando adoptando medidas

y deje de ser una mera aspiración en definitiva medidas

de una igualdad real y efectiva y velar por esa igualdad de oportunidades a la que hacía referencia el señor maneiro sin que sirva de preferente puesto que estoy de acuerdo en esa afirmación porque ya sabe usted y

coincidimos por las posiciones que mantiene upyd y el partido popular que son generalmente radicalmente diferentes en los temas sectoriales hay que impulsar la presencia de la vida de las mujeres

políticas de promoción económica y empleo que favorezcan la reinserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables y entre ellos obviamente el de muchas mujeres hay que avanzar también decididamente como se ha dicho lo ha dicho también la señora celaá

a través de la educación que tiene un papel fundamental en avanzar hacia esa corresponsabilidad que es una de las asignaturas pendientes hay que avanzar también en la conciliación de la vida familiar personal y profesional y sobre todo

solo de mujeres y que hay que involucrar sin ninguna duda a los

sus funciones están recogidas muy claramente en el artículo tres y depende

transversal por lo tanto señora urrea lo que usted pretende está absolutamente garantizado con la estructura de emakunde

vasco de la mujer que tenemos actualmente y que lleva desarrollando un trabajo de forma ininterrumpida durante tantos

existe por lo tanto coordinación entre los diferentes ámbitos institucionales y existe esa transversalidad a la que usted hacía referencia o mejor dicho

en su iniciativa justifica la creación de una vicepresidencia que

que tengan que ver con la igualdad y esa transversalidad tenemos la ley de igualdad también la ley cuatro barra dos mil cinco para la igualdad de hombres y mujeres

dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en los distintos ámbitos está también como se ha dicho aquí en vigor

que recoge de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos en materia de igualdad y se recogen acciones específicas en distintos ámbitos este plan fue presentado

de emakunde la pasada legislatura estará sometido a la evaluación correspondiente y también en relación a las previsiones legales correspondientes también este ejecutivo elaborará un nuevo plan de igualdad sí tengo que decir que en las enmiendas presentadas no he entendido la referencia

de euskadi permítame señora celaá que no la entienda porque estaba previsto en el calendario legislativo de su gobierno la legislatura pasada como usted bien recordará y como fue miembro

su materialización del dos mil diez y se aplazó se aplazó según el partido socialista y por el propio ex lehendakari que también está aquí presente por razones económicas y se nos decía entonces

en la que estábamos viviendo y los problemas que se estaban tendiendo no permitían que dicho consejo saliera tal

iniciativas específicas en esta cámara y quiero recordar una proposición no de ley

dijimos que ya había una comisión consultiva

posibilitaba la participación del movimiento asociativo en la comunidad autónoma del país vasco que es lo que tiene previsto

este consejo vasco de mujeres se dejó en suspenso por las restricciones

aconsejaban nos decía entonces el ex lehendakari patxi lópez que requiere de importantes recursos

que la dotación presupuestaria era excesiva y que había que posponer esa iniciativa y hacía referencia a esta comisión consultiva que yo he mencionado por lo tanto

que ustedes que han tenido responsabilidades de gobierno que pudieron crear en su momento

de mujeres apelaran al momento económico que estábamos atravesando y que

a crear este órgano cuando usted sabe que las circunstancias económicas son también muy delicadas y que este gobierno se va a ver obligado

lo ha reconocido y lo ha anunciado en reiteradas comparecencias pues a realizar ajustes muy severos

que me sorprende en cierta medida que también el partido nacionalista vasco en esta ocasión

a ese planteamiento del partido socialista porque en la misma proposición no de ley

el partido nacionalista vasco y en este caso la portavoz que llevó este tema fue la señora arregi

de este órgano será por esas cosas de que ahora los que estaban en la oposición están en el gobierno y los que están en el gobierno estaban en la oposición en definitiva nosotros finalmente sí vamos a apoyar la enmienda no habíamos presentado una enmienda porque nos parecía que no tenía ningún sentido la iniciativa planteada inicialmente

de transacción en el sentido de que consideramos que las estructuras que tenemos en la comunidad autónoma vasca funcionan muy bien tienen un recorrido y además están plenamente identificadas por la ciudadanía vasca se garantiza la transversalidad y se promueven políticas

que garanticen esa igualdad real efectiva y esa igualdad de oportunidad de mujeres y que se subsanen
esas diferencias que existen todavía desgraciadamente hoy en muchos ámbitos concretos nada más y muchas gracias eskerrik asko

muy brevemente desde mi escaño hay un factor clave

la voluntad política en primer lugar con un recorte tan brutal como el que vamos a sufrir la voluntad política habla por sí sola

para nosotras emakunde en los últimos años ha perdido gran capacidad de liderazgo en la promoción de las políticas públicas de igualdad en el gobierno y en el resto de instituciones vascas ese es nuestro principal problema a la hora

las estructuras no son suficientes si no se trabaja de un modo efectivo y real para llevar a cabo este tipo de políticas se tiene que tener una mayor toma de decisión la señora

que hay una estructura definida hay seis personas

para llevar o en el consejo que transmiten esa perspectiva de género a todo el ámbito de gobierno

hay que dar una mayor capacidad de decisión a esto incluso hay que dotar de un mayor personal técnico y establecerlo en un lugar de capacidad de incidencia política real nos vamos a abstener porque aunque el planteamiento

a cómo se van a dar estos acontecimientos se habla de contundencia ya veremos cuál es la contundencia con la que se va a cumplir esta enmienda transaccional

señor maneiro cuál es su concepto de igualdad cuando tiene en su partido qué lástima sin embargo le voy a dejar el mensaje teniendo el concepto en su partido que tienen de igualdad con un

diputado que está en la palestra ahora mismo por este tema

los hechos hablan por sí solos me gustaría finalizar

que realmente traducen aquello que he querido y he pretendido expresar en mi intervención

y que con nervios como ustedes habrán podido notar al ser la primera intervención lo he hecho estos son datos oficiales de la onu un organismo ajeno

niñas mikrofonoa mesedez barkatu el setenta por ciento de las personas pobres del mundo son mujeres o niñas tres de cada cuatro personas

de entre dieciséis y cuarenta y cuatro años son por violencia machista es decir setenta por ciento de mujeres asesinadas en el mundo y lo peor aún es que

mil millónes de mujeres una séptima parte de la población mundial

las políticas de igualdad no se trata de tener derecho a ser iguales se trata de tener igual derecho a ser diferentes

tras oír las intervenciones de todos los grupos

que hay para la consecución de la igualdad

y me encantaría que este nexo de unión que tenemos todos los intervinientes pudiera llevarnos a consensos a muy corto plazo

de los conceptos los que aquí se han hablado en relación con el tema de la igualdad en realidad

mucho más concreta y entonces podríamos hablar aquí de un montón de cosas

a centrarme en contestar a lo que ha sido la petición de eh bildu eta

dice la señora urrea que aprecian que emakunde ha perdido liderazgo en la sociedad será una apreciación muy personal porque todos los demás

emakunde lidera las políticas de igualdad aquí en euskadi

del consejo no son técnicos tienen rango de viceconsejeros y viceconsejeras volvemos a lo mismo la transversalidad existe existe con este tipo de funcionamiento y en este organismo ez diogu zentzurik aurkitzen legez besteko proposamen honi lehen esan dugun moduan

querer hacer mucho ruido y pocas nueces eta guk horrela

señora urrea que como premisa previa para hablar de vulneraciones de derechos y de desigualdades como premisa previa sería deseable conveniente primero que

las vulneraciones de derechos y las vulneraciones de derechos aquí que ha hecho una banda terrorista durante muchos años la banda terrorista eta

y ya yendo a lo concreto también podía centrarse en la desigualdad concreta

por la amenaza terrorista de eta nada más muchas gracias eskerrik asko

lehendakari señorías quiero empezar la intervención recordando

planteaba en materia de vivienda y vistos las estrecheces presupuestarias

nuestra propuesta de alguna manera hunde sus raíces en esa idea si bien no es el patrimonio del gobierno sino el patrimonio de los ciudadanos los ciudadanos que en su mayor parte viven o vivimos

en esta dirección se orienta nuestra proposición no de ley y decir que ese régimen de propiedad está regulado por la ley de propiedad horizontal que impone una serie de reglas

el deber de todos los propietarios de conservar en debidas condiciones de seguridad de estanqueidad de la accesibilidad los edificios

una exigencia que topa con un problema endémico que suele ser el de la morosidad la morosidad de los comuneros o copropietarios

y que por lo tanto plantean dificultades para hacer frente a esas obligaciones y mantener sus edificios sus inmuebles en las debidas condiciones

se da lugar a situaciones como digo de morosidad de morosidad creciente porque claro esto de la crisis afecta a todas las esferas de la vida en sociedad y cómo no a lo que es

donde el levantamiento de las cargas también está sujeto

me he basado en un informe sobre morosidad en comunidades realizado a nivel de toda españa por el programa de lucha contra la morosidad en el que interviene el colegio de administradores de madrid acción legal logalty arbitralia el derecho grupo francis lefebvre mapfre instituto de mediacion inmedia

y fijaba una estimación para el dos mil doce puesto que esto de la crisis va cogiendo un carácter exponencial

el informe distingue entre diversos grupos de morosos plantea que hay un cuarenta por ciento de propietarios morosos que obedecen a una causa selectiva es decir pagan sus facturas pero

las derramas o las cuotas de propiedad suelen ser una de esas últimas facturas que se pagan y a este grupo del cuarenta por ciento pertenece según este informe parte de la morosidad

y normalmente no lo hacen amparándose en diferentes causas que carecen de fundamento jurídico pero se amparan en todo eso esto

el tercer grupo lo constituyen los insolventes reales las personas que realmente no pueden hacer frente

sus cuotas para los gastos generales y menos para derramas de gastos extraordinarios y el doce por ciento restante lo constituye un grupo heterogéneo de promotores inmobiliarios y entidades financieras que sin embargo siguiendo con este informe

adolece ciertamente nuestra propuesta de la dificultad de no tener datos digamos ceñidos a nuestra realidad al ámbito vasco a la comunidad autónoma estamos hablando

de un espectro mucho más amplio y por lo tanto reconozco que esta es una dificultad pero precisamente por eso los tres pasos que propone la iniciativa para ir en primer término estimando realmente si este problema este fenómeno qué alcance tiene en euskadi a lo mejor resulta que aquí esto no pasa lo que ocurre es que la videncia empírica dice que las prácticas bancarias tienden a generalizarse y por eso tiendo a pensar que

también dice el informe que el comportamiento de las entidades financieras es desigual no todas actúan de este modo hay algunas que son cumplidoras y otras en cambio no lo son

sabemos también que esta actitud en el caso de las entidades financieras que mantienen esta situación de morosidad por supuesto no se deben a una situación deinsolvencia

esto podríamos presumirlo en algunos casos pero en el caso de las entidades financieras no cabe presumir un problema de insolvencia y este es el principal motivo de la iniciativa

asumir y cumplir sus obligaciones y sus compromisos cuando no lo hacen es porque una vez más están sirviéndose de una situación abusiva de una situación dominante a la que tendremos ya que acostumbrarnos y aunque

los tenemos que aceptar resignadamente porque tampoco se puede hacer muchos más por eso esta iniciativa lo que propone es

lógicamente los poderes públicos no debieran de consentir que situaciones abusivas se puedan estar dando porque además está menoscabando el patrimonio de los ciudadanos como digo

que no tienen por qué ser simultáneos sino que en primer lugar se plantea que se haga una estimación bien a través del observatorio en colaboración con los administradores

inferirse más o menos cuál es la magnitud y el alcance del problema si es que lo tenemos en segundo lugar visto que realmente el problema existe

a la realización de obras necesarias en las comunidades el segundo paso sería exhortar a las

a que por una vez hagan las cosas como es debido y que no sometan al resto de copropietarios de una finca en la que tienen sus propiedades

a demorar las obras necesarias que haya que hacer esto posiblemente por sí mismo contiene elementos suficientemente disuasorios entiendo para que por mor de la imagen corporativa las entidades financieras si están en esta situación de morosidad y de incumplimiento probablemente

y terminarían finalmente por llevar a cabo las obligaciones que tienen pendientes con la comunidad de la que forman parte y finalmente viene el tercer paso que entiendo que

en cuatro líneas no se explica la naturaleza del mismo y además esto de hablar fondo ya sé que pone los pelos como escarpias

pero quiero decirles señorías que no se trata ni mucho menos de plantear un fondo en términos de creación de partidas presupuestarias adicionales

un gasto mayor se trataría en todo caso y esta sería un poco la fórmula de que a partir de las cuantías que se manejan en rehabilitación estas

pudieran revestir también el carácter de fondo de maniobra de un fondo de maniobra colectivo o un fondo de liquidez a efectos de que una comunidad solo en los casos que haya que llevar a cabo una obra extraordinaria una obra necesaria

o bien a veces porque hay ordenes de ejecución de los ayuntamientos que obligan a las propiedades a llevar a cabo obras

bastantes fenómenos de meteorología extrema no es infrecuente que caigan cascotes que caigan cosas que haya que balizar la vía pública y ordenar seguidamente que se hagan obras si esto ocurre y realmente en la propiedad hay un moroso un moroso importante que porque tiene unos pisos que se quedó con ellos o porque tiene una sucursal que está vacía que por procesos de absorción no le da

ninguna utilidad y no está abonando sus cuotas eso plantea un problema entonces ese fondo actuaría

a modo de un crédito a favor de la comunidad que tienen que emprender esa obra y como digo son obras necesarias o urgentes no hablo de obras suntuarias o de mero ornato debidamente necesarias con una garantía la garantía de la cesión del crédito

que las comunidades pueden emprender acciones y de hecho existe un procedimiento que es el procedimiento monitorio que se introdujo en la ley de enjuiciamiento precisamente porque los colegios de administradores lo planteaban luego no se hace mucho uso de él pero esa sería la garantía la cesión de crédito

reclame al banco si realmente el banco la entidad financiera se hace

pues el gobierno con toda su solemnidad podría recabar para sí

el dinero es verdad que esto no tiene por qué ser solo en los casos que aquí exponemos

de morosidad distinta lo que pasa es que cuando fuera por casos de insolvencia esa garantía ya no tendría

una garantía por lo tanto no se trata de crear un fondo ex novo sino

se suelen habilitar para actividades de rehabilitación como digo nada de gastos generales no se trata de obras suntuarias sino solamente

inmuebles que por su antigüedad no tienen las condiciones de accesibilidad que pueden necesitar en un momento dado

unas razones o por otras necesiten mejorar su accesibilidad esta es en definitiva la intención del fondo que planteamos que como digo no supondría traer dinero

en la cocina que se hace antes de estos momentos para financiar a los bancos faltaría más no tiene para nada una finalidad de ese tipo por lo tanto el espíritu que anima a la propuesta es que no se sigan dando situaciones de abuso que permita por otra parte

a través de la rehabilitación pertinente lo cual también coadyuva a la generación de actividad económica y sobre todo porque resulta inaceptable que viniendo

obligaciones como digo una parte de las debilidades que tiene la propuesta es que desconoce el alcance a día de hoy que puede haber esto en euskadi ojalá nos encontremos con que este no es un problema no es un fenómeno que ocurre pero

está ocurriendo otra debilidad que tiene la propuesta es que esto realmente no existe en ningún otro lado en ninguna otra cámara o asamblea autonómica se ha planteado esto y mucho menos en el congreso pero lo que podía ser una debilidad

un ejemplo a seguir sobre formas de corregir situaciones de abuso y que contribuyen al bien común

faltan políticos como usted tan sinceros que efectivamente dicen lo que piensan y que incluso cuando van a defender una iniciativa no demasiado

las debilidades de la misma que lo positivo de la iniciativa original eso le honra

en este asunto se lo digo con toda humildad un error que es algo tan sencillo como haber hablado antes con el resto de grupos para haber entendido por ejemplo mejor lo que usted planteaba en ese tercer punto que efectivamente ninguno de los grupos

pero si hubiéramos tenido tiempo para hablar del asunto a fondo quizás entre todos habríamos sido capaces de plantear una enmienda

conjunta para resolver un problema que parece ser que existe aunque usted por momentos dudaba de que existiera y poder poner entre todos

para resolverlo que yo creo que era la intención que usted tenía al plantear esta

nos ha explicado la iniciativa nos plantea la problemática de las entidades financieras que han venido dejando de pagar o directamente no pagan los gastos comunes

propietarios bien como consecuencia de que existen sucursales cerradas que no pagan o bien como consecuencia de los desahucios en concreto pisos que han pasado a manos de los bancos y que tampoco pagan y por lo tanto y como consecuencia de eso se incrementan las deudas

y falta de recursos ante esta situación que parece existir

vista su iniciativa original lo que hemos hecho ha sido plantear una enmienda de totalidad en la que como usted habrá visto exponíamos

con dos de sus tres puntos no así con el tercero por eso

sus primeros dos puntos básicamente iguales y añadíamos un tercero proponíamos instar al instituto vasco de consumo a que articule el mecanismo adecuado para informar

para reclamar a las entidades financieras los importes debidos nosotros no estábamos de acuerdo efectivamente al igual que el resto de grupos con esa propuesta de crear un fondo porque entendíamos que lo que usted nos proponía es que nosotros pagáramos las deudas de los bancos después ha explicado que no es eso podríamos haberlo hablado antes

y firmar quizás una transaccional entre todos en todo caso

sí que hemos firmado una enmienda transaccional con el grupo nacionalistas vascos creo que es perfectamente razonable y creo que es perfectamente votable también por su

un informe sobre la problemática de la morosidad en las comunidades de propietarios generadas por los impagos por parte de las entidades financieras porque efectivamente no existen datos precisos

en el segundo punto lo que proponemos es instar a las entidades financieras lógicamente que pudiesen estar provocando estas situaciones de morosidad a que de modo inmediato paguen lo que deben y en tercer lugar a propuesta del grupo nacionalistas vascos lo que proponíamos era instar al gobierno vasco

de las pautas que deben seguir ante la morosidad para reclamar los importes debidos de modo general y a las entidades financieras en particular en conclusión esta es la enmienda transaccional que nosotros hemos alcanzado y que efectivamente propone lo

proponía soluciones concretas soluciones razonables soluciones realizables para corregir

que se vienen produciendo en nuestra comunidad nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

yo señor itxaso tengo que reconocerle

porque como cuando leí la iniciativa no daba crédito a lo que estaba leyendo

alguna justificación primero de la propuesta y luego de lo que usted propone y la justificación de lo que usted propone hoy

la deuda de los bancos con las comunidades de propietarios que yo le tengo que reconocer usted decía ojalá no haya ninguno yo le tengo que reconocer que no conozco ninguno pero tampoco he conocido durante años pasados a ninguno y usted nos dice

otro porcentaje muy importante de los que se declara insolvente por la crisis económica y luego hay un doce por ciento entre promotores y bancos

que algún banco en algún sitio en españa debe alguna deuda de una comunidad de propietarios

del impago de las deudas de comunidades de propietarios si es que existe algún banco que no paga sus deudas a una comunidad de propietarios

porque ese banco probablemente perdería los clientes ipso facto porque claro tener el dinero en un banco que no paga sus deudas de comunidad de propietarios

no es un buen precedente para trabajar con ese banco

usted en su justificación nos dice que además de observar el comportamiento antisocial

de los bancos y que muchas veces se han visto salvados con el dinero público usted nos propone que los supuestos impagos de los bancos a las comunidades de propietarios

y nosotros le tenemos que decir que estamos radicalmente en contra no sé si el partido socialista está pensando en trasladar esta propuesta al congreso de los diputados

no tengo ninguna duda del escándalo que sería

verdad que un gobierno del partido popular le esté planteando crear un fondo y luego vamos a hablar de cómo lo ha matizado usted

crear un fondo para adelantar el pago de las deudas de los bancos a las comunidades de propietarios habría que oírle al señor rubalcaba y compañía

pero es que usted nos ha dicho bueno he puesto un fondo pero en realidad

se trata de quitarlo el destinado a las subvenciones de rehabilitación

es decir usted nos está diciendo que como hay un banco que le debe dinero a la comunidad de propietarios vamos a pagar el dinero del banco con la subvención para toda la comunidad de propietarios y le dejamos a la comunidad de propietarios sin la subvención para la rehabilitación

todavía nos gusta menos que su propuesta inicial todavía menos

es incomprensible las comunidades de propietarios existen hace mucho tiempo

yo no sé si usted sabe que las comunidades de propietarios y sí lo sabe o en este país un privilegio a la hora de cobrar sus deudas

usted sabe que se le puede reclamar al anterior propietario y al nuevo usted sabe que la vivienda o el local queda vinculado al pago

usted sabe porque la ley así lo dice que incluso el embargo es automático si lo pide la comunidad de propietarios en el juzgado cosa que no ocurre en ningún otro caso sin presta aval ni fianza de ningún tipo basta pedirlo en el juzgado pero es que además todos sabemos

ni siquiera necesitaría usted ir al desahucio del banco que es que ya es para nota lo que estamos hablando aquí

usted sabe que si usted le quiere embargar a un banco por una cantidad de dinero

por si acaso en el propio banco en la caja del propio banco no tiene dinero

que nos está planteando un problema que no existe porque si nosllega a plantear usted el problema de las comunidades de propietarios que tienen copropietarios que no pagan evidentemente es un problema que ha existido siempre y hoy probablemente más

que nos diga que destinemos a pagar las deudas de los bancos dinero público nuestro me da igual si quitando lo de la subvenciones para rehabilitación de viviendas o creando un fondo nuevo

estamos en radical desacuerdo en financiar a los bancos con dinero público o con más dinero público o en este caso con el dinero público destinado a subvencionar rehabilitación de viviendas

que además tampoco se le dan a cualquiera sino a los que cumplen

es decir los que no tienen unos ingresos muy superiores porque usted ha estado en el gobierno vasco

que además hay que hacer un estudio oiga es que yo me opongo a que se gaste un euro en hacer un estudio en esta cosa porque claro si usted nos dice

no hay ninguno pero no sobra el dinero

estudios sobre un problema que no existe pero le voy a decir lo peor porque usted nos dice que el gobierno vasco adelante el dinero y luego el gobierno vasco se subrogue en la postura de la comunidad de propietarios

el crédito como le he dicho es privilegiado el procedimiento

el embargo es automático si el gobierno vasco pagara por adelantado y se subrogara en un crédito

el gobierno vasco no tendría un crédito privilegiado el gobierno vasco no podría pedir el embargo automático del banco porque eso solo lo puede hacer la comunidad de propietarios porque para eso se lo da a la comunidad de propietarios

ustedes son muy progresistas la banca es muy mala pero nosotros no estamos dispuestos a financiar a la banca con el dinero público y menos para esto

en la cocina previa ya vi que había esas reticencias y

pero tenía necesidad de explicar lo que proponíamos y a fin de cuentas

tampoco debía de ser un despropósito tan general porque el grupo bildu suscribe los dos primeros puntos el propio señor maneiro estaba de acuerdo también en los dos primeros puntos y por lo tanto alguna racionalidad tendría cuando una parte de la cámara asumía esos postulados sin embargo hacía observación sobre la cuestión del fondo pero quería

esto de poder explicar las cosas no es fácil porque realmente uno no termina de hacer un desarrollo sin que alguien se adelante y demás y ahora que se incorpora

pero verá coincidía su enmienda en los dos primeros puntos con la iniciativa que además no estaba

de templar gaitas yo no lo podía ofrecer a usted una transacción en la que estuvieran los dos grupos porque sabía que estaba condenada de ante mano entonces que en estas circunstancias además de por problemas de agenda que me han impedido también atender todo esto pues que a lo mejor sabiendo que suscribían ab initio estas cuestiones no habría problema en secundarlas pero le reconozco a usted que he

no hay nada personal créame en cuanto a bildu le agradezco desde luego el apoyo que nos da a esto y por supuesto vamos a plantear que se haga por puntos y anuncio si es posible supongo que el reglamento lo aceptará el tercer punto visto que no he sido capaz de convencer

efectivamente no he sido capaz pero no sé si eso tiene cabida o no estoy improvisando pero en principio va a ser pon puntos como no he convencido

no lo ve pertinente y por lo tanto lo retiraríamos sin mayor problema

de mas adelante ver si esa fórmula podría servir no solo para esto sino para otros supuestos porque creo que efectivamente atender digamos

un problema menor y por supuesto señor damborenea

argumentos y finalmente he terminado por desistir porque yo se realmente que esto no es una cuestión de argumentación

en sí misma es una cuestión de orientación

y de posicionamientos ustedes por ejemplo el partido popular ha planteado crear una lista

sin hacer abstracción de si esas personas han de venido en esa situación por imposibilidad

volver a ser sujetos inquilinos de un alquiler es decir ese es el planteamiento que tienen ustedes nosotros entendemos que hay toda suerte de situaciones

los que pudiendo no cumplen sus obligaciones y este era el espíritu de la propuesta no otro sin embargo ustedes en cambio no tienen problemas en minimizar

que contemplan al menos esa posibilidad para usted no existe pero realmente esto de

atentando contra la protección de datos pues se ve como verosímil y factible esa es lo que nos diferencia por eso tampoco me importa

definitivamente nosotros tampoco podemos compartir ese punto de vista que ustedes manejan porque está orientado está alumbrado por principios y conceptos distintos esta es la razón por lo tanto si es posible y si el reglamento lo permite además de hacer la votación por puntos que hasta ahí ya llego retiraríamos el tercero por falta de interés general

principalmente porque como decía la intervención inicial nosotros también en el fondo estamos de acuerdo con los dos primeros puntos

no sé si es cierto que el tono muchas veces tiene su importancia pero más importancia tiene los argumentos las propuestas prácticas y en este caso

las propuestas prácticas ya que con

no me lo atribuyó sino que va en la línea de lo que upyd marcaba dar esa información entendemos que es más completo que el aprobar únicamente los dos puntos por ello entiendo

que no lo han firmado para que pueda salir adelante besterik ez eskerrik asko

ha conseguido que alguien entienda que tenemos un gran problema con los bancos que no pagan a las comunidades de propietarios además de usted

por lo tanto su misión imposible no lo ha sido para tanto alguien le ha convencido de que efectivamente tenemos

y esto de que retiro el tercer punto yo no sé si cabe o no cabe retirar una iniciativa a cachos hasta ahora no lo habíamos visto en este parlamento pero bueno la presidenta y el letrado nos informarán

de morosos usted coge y viene aquí y nos dice que hay un veintidós por ciento según su informe de jetas creo que les ha llamado usted jetas que no pagan a las comunidades de propietarios porque no les da la gana y a usted le parece mal por ejemplo que se haga una lista de jetas morosos a las comunidades de propietarios para que las comunidades de propietarios sepan quiénes son a usted le parecería mal

rápido desaparecería si es que existe alguno si es que existe alguno le parecería mal

publicar las listas de jetas morosos en esta materia o en la fiscal otra cosa es que en fin cumpliendo las leyes y como usted dice la de protección de datos

también están los jetas que viven de hotel en hotel y no pagan en ninguno ya sabemos pero nosotros creemos que uno de los derechos de los ciudadanos es saber quién es un jeta y prevenir

y no me diga que para mí no existe este problema

aparezca que no hay ninguno usted no conoce en el país vasco ninguna comunidad de propietarios a la que le deba ningún banco las deudas de la comunidad y yo tampoco

no sé si a alguien más le consta ha convencido algunos de que sí tenemos un gran problema y vamos a hacer una transacción que nosotros vamos a apoyar pero vamos a apoyar porque dice que el parlamento vasco insta al observatorio vasco de la vivienda a que haga un informe sobre la problemática de la morosidad de las comunidades de propietarios pero vamos a apoyarla para ver si este observatorio sirve para algo porque claro no había detectado este problemón

entonces la vamos a apoyar para ver si es verdad que este observatorio vasco de la vivienda por primera vez consigue detectar un problema y le damos solución muchas gracias

señora presidenta y brevemente la verdad es que sí que es cierto que hemos llegado a un acuerdo mi grupo como proponente y los dos enmendantes el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco de un texto común en relación con este tema

contenido de la proposición no de ley en relación con la comunicación sobre economía social a esta cámara

en comisión del señor consejero de empleo y políticas sociales

traer a primera línea del debate y del protagonismo parlamentario a la economía social y a su necesidad de promoción de visibilidad tantas veces reclamada

con la economía social se puede jugar el fenómeno que suponen las empresas de economía social

un posicionamiento público decidido hacia su defensa hacia su fomento y eso está claro yo creo que lo asumimos todos y lo vemos todos como positivo nuestro grupo ha presentado

parlamentaria también la comparecencia de la directora de economía social con el ánimo absolutamente más positivo más constructivo más decidido por avanzar desde el comienzo

la dimensión de la economía social además en estos últimos tiempos se refuerza se incrementa con la aprobación de la ley cinco barra dos mil once de economía social y ello es una buena noticia también se le aparece al gobierno vasco

que saber gestionarla en euskadi sin duda con un sector además ahora más poderoso y preparado

con muchas características en europa y en el mundo en relación con esta cuestión

la comparecencia parlamentaria del señor consejero en la que se exponían los objetivos del departamento de empleo y política sociales para la actual legislatura

también abogó por la difusión de la economía social y de la responsabilidad social empresarial y por la consolidación de estructuras asociativas y representativas de la economía social y solidaria

y otra serie de empresas y de colectivos de economía social

y la experiencia también práctica teórica y normativa del fenómeno cooperativo y de la economía social en general han hecho que en estas dos legislaturas pasadas

en el parlamento en sendas comunicaciones del gobierno los aspectos más destacados sobre la situación de la economía social en euskadi y sus necesidades de fomento

importante experiencia coincidió en los últimos años con la aprobación además de la ley sociedad cooperativa pequeña y con la presencia

de representantes de las distintas expresiones de la economía social de las instituciones además expertas en economía social universitarias e investigadoras del país vasco es decir el parlamento vasco ha seguido de cerca el fenómeno ha hecho propuestas porque

y con su desarrollo y pensamos que debe seguir en esa línea es importante también

que la ley de cooperativas de euskadi aunque con reformas puntuales puede y tenemos que reflexionar

no solo al fenómeno cooperativo sino al conjunto de la economía social eso está ahí será un elemento de reflexión que todos valoremos en orden al acuerdo no se ha establecido un plazo cerrado para la confección

que antes de finalizar este año se pudiera reeditar ese compromiso parlamentario con la economía social y abordar desde el parlamento esa cuestión

entienda cuál es la dimensión desde su punto de vista de ese fenómeno y la posibilidad de fomento de difusión de visibilidad de la economía social y por ello sencillamente hemos presentado

y la enmienda de transacción es la siguiente el parlamento vasco reconoce la relevancia del movimiento cooperativista y de la economía social en general

y el segundo planteamiento que es el concreto ya sobre el trabajo que encomendamos

que describa y desarrolle la situación de los distintos ámbitos de la economía social en euskadi y que exponga y detalle las medidas de fomento impulso y difusión

puedan seguir afianzándose e incrementándose en nuestra sociedad simplemente agradecer a los grupos enmendantes sus aportaciones y la sensibilidad con la que

para expresar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado los socialistas estamos a favor de la economía social como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones y como ha sido testimonio dado por el gobierno que hemos presidido la legislatura pasada

en esta posición pero como el señor barrio es uno de los parlamentarios más activos en esta materia y ha expresado y ha comentado

barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias presidenta bueno para agradecer a los grupos

a esta iniciativa pues instar al gobierno ya que no hay un plazo

a lo largo de este año podamos hacer ese trabajo y desde luego pues tampoco decir que no nos cabe ninguna duda a nosotros que cuando hablamos de economía social

está dentro de los conceptos de economía solidaria de tercer sector es decir es una cuestión amplia

han sido hechas para favorecer esa cuestión también hemos preguntado sobre eso al gobierno yo entiendo que todo es positivo

y en ese sentido pues economía social solidaria tercer sector pues bueno de todo eso tendremos que hablar